eta zer da hau zehazki qué son los puntos

para hijos e hijas de padres separados para hijos e hijas o personas menores de edad en situación de riesgo para personas que tienen que acudir ahí

cuando hay también menores que han sufrido cualquier tipo de agresión para controlar las visitas para hacer visitas tuteladas para hacer

tener ayuda y orientación psicológica y con esto hacer informes a los diferentes juzgados para ver si efectivamente el planteamiento que se hace se tiene que mantener o no

esta comparecencia en el dos mil trece se hicieron otra serie de estudios en relación con la situación del servicio con cómo se estaba dando con qué carencias tenía o qué era lo que había que regularse y lo que se puso de manifiesto fue que en el dos mil trece había más de mil personas usuarias y que había más de treinta y seis mil actuaciones pero en el dos mil trece

eran exactamente los mismos que los que había en el dos mil nueve

uno en gipuzkoa y otro en araba el ararteko hizo un informe recogiendo las quejas de los usuarios en el dos mil trece y lo que

como cuestión importante era que teniendo en cuenta el servicio que había y los centros que había había un riesgo de saturación del servicio que había un gravísimo problema de disponibilidad que había un gravísimo problema de distancia y que había un gravísimo problema de retrasos en los

y planteó que había que hacer una evaluación para adecuar esto a la situación

oso toki gutxi daudela y no solamente eso sino que en algunos centros no hay espacio no hay sitio

y una cuestión que era importantísima y que por eso nosotras planteábamos que se hiciera ese análisis es que había que hacer largos desplazamientos con los menores desde los lugares de residencia hasta el lugar donde se hacía el servicio esto

para hacer uso de este servicio obligatorio por imposición del juez se tenía que trasladar a bilbao lo mismo si vivía en durango o si vivía en tolosa se tenía que trasladar

por lo tanto lo que era necesario era hacer un análisis de la situación ver qué es lo que pasaba e intentar adaptar el servicio a las necesidades de los lugares y de los usuarios

que efectivamente se está haciendo esto ya sabemos que como consecuencia de esta

se han empezado a hacer gestiones en tolosa en gernika

lugares para poner en marcha este servicio conocemos que se está haciendo esa evaluación que incluso en algunos sitios ya se tienen los locales y se están iniciando

vemos que la propuesta que hicimos ha tenido sentido ha tenido consecuencias y ha tenido resultado positivo pero

y como no nos parece suficiente por eso pensamos que el acuerdo que hemos logrado que lo que dice es precisamente que se haga esto que se siga poniendo en marcha que no se deje y que se termine de hacer esta adecuación

decirle a la señora consejera que sabemos que está haciendo el trabajo de adecuar y de poner en marcha esto pero

vamos a darnos un tiempo prudencial a ver cómo se desarrolla pero que evidentemente desde eh bildu por la importancia que tiene y por

muy atentas para ver cómo se desarrolla para pedir y en su caso si fuera necesario exigir que se desarrolle y para que lo que hoy acordamos más pronto que tarde sea una realidad porque es en beneficio de muchas personas de muchos usuarios y sobre todo de personas menores de edad
que son las verdaderas destinatarias y las verdaderas usuarias de este servicio besterik ez eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia

andrea sailburuok compañeros parlamentarios compañeras parlamentarias la parlamentaria

una propuesta no de ley sobre los puntos de encuentro familiar que ella ha llamado

es muy sugerente y lo ha dicho todo ella no tenemos mucho que decir vamos a ser muy breves y solamente vamos a recalcar dos asuntos que nos parecen importantes lo primero es que

han andado como se suele decir como pollos sin cabeza prácticamente hasta el dos mil siete donde un conjunto de leyes intentaron organizar la financiación las condiciones materiales adecuadas

la neutralidad de los informes de los profesionales mediadores la rotación y otros ratios inadecuados de profesionales que participaban en su gestión

a estos puntos de encuentro familiar estoy refiriéndome como ya se ha dicho al decreto ciento veinticuatro de dos mil ocho del uno de julio regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la comunidad autónoma vasca

en donde se plantea la responsabilidad del departamento de justicia por fin y la ley doce

del cinco de diciembre donde los puntos de encuentro familiar ya son reconocidos como parte del catálogo de prestaciones

y esto sí es interesante del conjunto de planteamientos que ha hecho la parlamentaria jone yo no me voy a repetir solamente quiero plantear dos asuntos cuatro asuntos muy breves nos parece importante a elkarrekin podemos

de estos puntos de encuentro familiar sin duda un avance importante del departamento de justicia en organizar la mediación en la forma de resolver problemas en este caso las relaciones y los derechos civiles de niños niñas y adolescentes en relación

y otro tipo de relaciones autorizadas entendemos que este primer punto que tiene que ver con mejorar la agilidad y la accesibilidad pareciera importante

donde haríamos un diagnóstico de la cercanía a las demandas conocidas ochocientos ochocientos dos demandas ha habido el año pasado a los puntos de encuentro familiar lo que pasa que bajo el punto de vista de estas demandas se saturan y se concentran como es conocido

planteando problemas de accesibilidad se pueden utilizar sistemas como cita previa y otros que ya se utilizan en algunos puntos de encuentro que no son todos idénticos así pues parecería interesante hacer un diagnóstico de la suficiencia de centros en el conjunto de los tres territorios parecería importante hacer un análisis de la adecuación de las instalaciones teniendo en cuenta que algunos dueños provienen de

parecería importante analizar la cercanía a las demandas conocidas no vamos a poner centros donde no es necesario y sí es bueno poner centros donde las demandas son importantes o sea discriminar el dato hay ochocientos dos demandas de dónde vienen las demandas dónde han estado los jueces que han organizado esas órdenes judiciales

en marcha analizar las causas de los retrasos no vaya a ser que el problema no esté en los puntos de encuentro familiar y los problemas

a los análisis del propio ararteko en relación con la rotación y la movilidad de operadores judiciales para tomar decisiones a los puntos de encuentro familiar según me refieren compañeras y compañeros que son profesionales de mediación o jueces de paz que han intervenido en el proceso no hay problemas escasamente

para que los derechos civiles y los encuentros de los niños niñas y adolescentes estén garantizados

está en el mismo proceso judicial por lo tanto habría que hacer un análisis del tema también otro asunto que no se ha comentado es mejorar la movilidad

que ha habido problemas en varios puntos de encuentro familiar para su accesibilidad en algún caso

el primer punto pues insisto es mejorar estudiar la agilidad y la accesibilidad

o no de hacer centros nuevos como propone nuestra proposición no de ley felizmente consensuada entre todos los grupos políticos

tendremos tiempo tanto en la comisión de trabajo y justicia como en distintos instrumentos de analizar el propio

de todo el proceso judicial estoy hablando de la movilidad de los operadores jurídicos estoy hablando de la suficiencia de recursos ahora mismo solamente

dimitido no puedo plantear el tema pues parecería que hay un montón de insuficiencias no tanto en el marco de euskadi sino en el marco del estado español para abordar con celeridad

hay varios asuntos que tienen que ver con la justicia del menor pero tienen que ver también con temas

adolescente así pues estoy hablando de la suficiencia de recursos humanos para algunas tareas específicas que ya se han mencionado en la comisión

de la coordinación importante coordinación de fiscales jueces y procuradores en los procesos de toma de decisiones para iniciar los puntos de encuentro familiar

es fortalecer la cultura de defensa de los derechos civiles de niños niñas y adolescentes adn de este parlamento y de nuestro gobierno

es fortalecer lo que se suele llamar culturas de mediación en la resolución de conflictos este tema de la cultura de mediación en la resolución de conflictos donde los puntos de encuentro familiar un prototipo lo vamos a volver a discutir para nuestro modelo de prisiones el modelo de transferencia y de gestión de las prisiones en euskadi lo vamos a tener que discutir en los modelos de justicia restaurativa

en los modelos de la mejora de los procesos judiciales las culturas de mediación para elkarrekin podemos son elementos fundamentales en

sino también conflictos en el mundo judicial en el mundo

fortalecer culturas de mediación de qué estoy hablando estoy hablando que se desarrollen en los procesos de formación para todos los operadores jurídicos

neutrales que trabajan en los puntos de encuentro familiar de habilidades técnicas y procedimientos para buscar la máxima eficacia en la resolución de conflictos sin duda la resolución de conflictos mediante temas de mediación están siendo un éxito en los procesos judiciales del menor en euskadi

infanto juveniles quiero decir los problemas de menores se han resuelto en un porcentaje

técnicas de mediación en la resolución de conflictos estas culturas se desarrollan se fortalecen en los puntos de encuentro familiar apoyamos esta iniciativa de la parlamentaria jone goirizelaia

nuestra satisfacción por el de nivel de consenso logrado para intentar como bien decía jone

dar un impulso a que los puntos de encuentro se extiendan si es necesario mejoren la calidad y la suficiencia

la utilización de estos mecanismos de refuerzo de derechos civiles y refuerzo de técnicas de mediación eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

gracias señora presidenta miembros del gobierno y miembros de la cámara buenos días a todos es muy grato y es muy positivo subir a la tribuna para exponer un acuerdo que vamos a sacar

de todos los asistentes a este pleno ordinario y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que es un asunto

puede dar la impresión de que no es un gran acuerdo político de trascendencia política importante que no es una labor

en asuntos fundamentales pero si entramos al fondo del asunto y vemos que vamos a tratar de solucionar problemas que tienen nuestros menores yo creo que es donde radica la importancia de este tema los menores son el mayor tesoro que tiene esta sociedad como todas las

los que se reúnen o los usuarios de los recursos de estos puntos de encuentro familiar son menores especialmente vulnerables

que hace no muchos años a principios de la década de los dos mil los intercambios entre padres y madres separados que tenían que

magistrados sobre el régimen de visitas cuando hacían el intercambio de los menores en muchas ocasiones se realizaba en la puerta del juzgado durante el fin de semana en unos palacios de justicia en unos juzgados cerrados

aquello daba lugar a unas situaciones tremendamente desagradables que en muchas ocasiones acababan en denuncias en conflictos

esos procedimientos de ruptura de las relaciones de pareja o de ruptura de matrimonios que habían dado lugar régimen de visitas dictado por jueces y magistrados la cuestión ha evolucionado mucho efectivamente hemos trabajado en muy pocos años en positivo y los puntos de encuentro familiar funcionan bastante bien pero que no es la primera vez que este parlamento llama la atención del gobierno a la hora de hacer un estudio sobre el funcionamiento de esos puntos de encuentro familiar

y dotarlo de medios materiales y de medios personales adecuados nos encontramos con situaciones francamente

el mero intercambio de los menores para pasar fines de semana o periodos entre semana o periodos vacacionales con uno u otro progenitor visitas tuteladas encuentros que se deben llevar a cabo entre partes que tienen dictadas

cualificado altamente cualificado no solamente una cualificación técnica sino una cualificación humana

exquisita y extraordinariamente imparcial puesto que no solamente gestionan estos puntos de encuentro yo creo que esa gestión

que posteriormente se utilizan en los tribunales para las modificaciones de medidas para modificar los regímenes de visitas abrirlos o cerrarlos o en su caso

afortunadamente para denegar ese derecho de visita de alguno de los progenitores respecto de los menores esos informes son fundamentales no pueden estar

o con ausencia de medios materiales o con ausencia de formación o de sensibilidad por parte de los profesionales por eso hoy exigimos al gobierno que efectivamente lleve adelante ese estudio ese informe no solamente para abrir más puntos sino para ver dónde son qué tipología de asuntos se está estudiando en cada uno de esos puntos de encuentro familiar cuáles son las necesidades materiales

de sitios de descanso para que los profesionales puedan entrevistarse con los menores y ver la actitud que tienen cuando cambian de un progenitor a otro para esos periodos de descanso generalmente que pasan con ellos

las que tienen que plasmar en los informes que son el instrumento fundamental que luego utilizan

dictar las resoluciones sobre esos regímenes de visitas por tanto el estudio tiene que ser

a la que deben encontrarse esos puntos de encuentro familiar y sobre los medios materiales lógicamente que presupuestariamente son necesarios para su correcto funcionamiento y la segunda parte de la moción nos dice que exhortamos

las comunicaciones sobre esos regímenes de visitas tienen que ser más rápidas bueno no creo que sea una queja fundamental por parte

de quienes trabajan en este sector pero sí que es importante que no haya ni un solo caso en el que un despiste

un error del funcionario que tiene que hacerse cargo de esa tramitación o de esa comunicación pueda suponer un mal para cualquiera de los

obligados a acudir a este tipo de centros por lo tanto nos añadimos también a ese exhorto a los tribunales para que las comunicaciones al respecto con los centros de

sean lo más inmediatas posibles y lógicamente al gobierno para que les dote a todos ellos

este acuerdo que va a ser unánime de toda la cámara muchas gracias

miembros de la judicatura yo creo que esto no responde solamente a una preocupación de los miembros de la judicatura sino que también es una preocupación que mostró este parlamento ya en la anterior

recogió también el ararteko en su recomendación en el año dos mil trece yo he de reconocer que no ha sido difícil para los socialistas llegar a un acuerdo en esta cámara

que va a ser aprobada por unanimidad y yo creo cuando hemos

tan sencillo es porque creo que en este asunto compartimos todos la filosofía y la necesidad

diferencias cuando compartimos que son necesarios y la filosofía con la que se están prestando la

pues se hizo tomando en cuenta las circunstancias existentes en el momento

lógicamente hoy es diferente lógicamente también ha evolucionado desde esa puesta en marcha hasta hoy también ha habido evolución y cambios y no es que lo diga yo también lo recoge

pero sí es cierto que las circunstancias actuales pueden ser diferentes y que es necesario

oportunas de cara a que garanticemos que el servicio que se presta a las familias que han de acudir a estos centros

el ararteko en el dos mil trece como os decía definía estos servicios cuando estuvo analizando cómo funcionaban y cómo se regulaban estos centros que

a garantizar y facilitar con carácter temporal las relaciones entre hijos e hijas y su padre madre o custodio en situaciones fundamentalmente resultantes

en situaciones de violencia de género por ello los puntos de encuentro se configuran como unos recursos de apoyo para garantizar relaciones estables

con un objetivo claro y es de que se mejoren las relaciones paterno filiales bajo la perspectiva siempre de que el interés a proteger es el interés superior del menor tal y como nos decían en una comparecencia que se produce en esta sede parlamentaria por el responsable de los puntos de encuentro familiar del país vasco

eso ocupa exclusivamente un párrafo que como no es exactamente muy

de trece hojas es este párrafo que voy a leer dice no es un riesgo que afecte del mismo modo a todos los recursos habla del riesgo de saturación del servicio y en todos los momentos pues varía

siendo mayor lógicamente los fines de semana y en especial

vienen referidas fundamentalmente a esa necesidad de coordinación entre la judicatura la fiscalía y los puntos de encuentro familiar y hacen referencia también

que los informes que se emiten por los puntos de encuentro familiar hacia los juzgados

se tomen en cuenta con celeridad para las modificaciones que sean oportunas bien es cierto que ahí también afecta la celeridad aunque las partes intervinientes en el proceso tanto del padre como de la madre o de los custodios den respuesta a esas peticiones

datos que yo destaco del ararteko con respecto a la propuesta que hoy tenemos encima de la mesa uno

que tienen los pef en estos momentos en relación con la necesidad de una respuesta adecuada hay que analizarlos él lo dice y una necesaria coordinación entre los juzgados

entre los juzgados y los puntos de encuentro familiar en este sentido ya se pronunció la consejera socialista

al manifestarnos que se apostaba por una evaluación de los diferentes servicios vinculados a la administración de justicia estos también

y poner en marcha las medidas que fueran oportunas y no solamente lo dijeron sino que se pusieron manos a la obra y desde el departamento se ha realizado un análisis profundo de la situación de los puntos de encuentro familiar de nuestra comunidad ya lo han comentado algunos de los portavoces que me han

existentes hay un conocimiento contrastado de la situación lo que ha provocado que se inicien ya reuniones con representantes de diversas mancomunidades y ayuntamientos

en tolosa este último para facilitar la descongestión que en este momento se puede estar produciendo

en donosti con los nuevos puntos de encuentro que entrarán en vigor en dos mil dieciocho que entrarán en funcionamiento en dos mil dieciocho en durango y gernika

la red que actualmente existe en bizkaia y que son cuatro los puntos no tres cuatro los puntos actuales bilbao portugalete barakaldo y zalla

nos quedará después también el de vitoria y el de donosti y

además hay que tener en cuenta que en estos momentos está a punto de finalizar las obras para poder trasladar el punto de encuentro de bilbao hacia miribilla unos locales

del gobierno en este momento el departamento está a la espera de que los ayuntamientos

que ya se les han mandado porque lógicamente es el gobierno

ayuntamientos o mancomunidades quienes ponen la ubicación del local es verdad y alguien lo

si esto es así para qué es necesaria este primer punto de la transaccional yo creo que cada uno lo ve de una forma diferente jone decía que es que lo que se está haciendo no es suficiente

podemos decía que es que hay que darle impulso a la acción del departamento y el partido popular decía bueno

desde mi punto de vista yo creo que el propio acuerdo tiene un valor en sí mismo y es que tanto con esta declaración

el ararteko y respaldar el trabajo que ha puesto en marcha la consejera de trabajo y justicia es decir yo creo que en este momento lo que estamos poniendo de manifiesto aquí con nuestro primer punto es que todos compartimos

la necesidad de ese análisis que ha realizado el departamento de trabajo y justicia se articulen los medios que sean necesarios para adecuar ese servicio en términos de calidad y se preste a las familias de nuestra comunidad y eso es lo que está haciendo

a la actuación que desde su departamento se está realizando y yo creo que eso es importante

se ponen en marcha para cubrir las necesidades que tienen los ciudadanos de nuestra comunidad

cuando creemos que tienen que hacerse cosas que no se están haciendo sino también cuando compartimos la forma de hacer y es que los socialistas apostamos y yo creo que todos ustedes también porque van a votarlo hoy

no es otra que la evaluación continua de políticas públicas que hagan que tengamos unos servicios eficaces eficientes y de calidad y que además respondan a las necesidades de nuestros ciudadanos hemos coincidido en un segundo punto también en recomendar a la judicatura

que se producen en la comunicación a los puntos de encuentro familiar y que desde luego leyendo el informe del ararteko se ven perfectamente donde se producen las distorsiones yo creo que hacemos nuestra

intentar que haya una mayor celeridad o una mayor agilidad a través de los medios que sea posible reasignación de funciones de recursos entre los diferentes juzgados les menciona el ararteko

todo lo que sea necesario y que este en su mano porque todo ello va a redundar en beneficio de las comunicaciones que necesariamente se deben producir de forma tutelada vigilada o intermediada

el tiempo para la normalización de las mismas y la necesidad de no tener que seguir

familiar finalizar esta intervención en estos últimos veinticinco segundos creyendo que es importante que pongamos en valor cuando este parlamento alcanza acuerdos unánimes en tema como este que no son ni más ni menos importantes sino simplemente

del año dos mil cuando por primera vez este parlamento aprobó por unanimidad una sobre la puesta en marcha de programas de punto de encuentro familiares que pretendía impulsar y garantizar el desarrollo de los denominados puntos de encuentro como un instrumento al servicio de la mediación familiar y de la prevención de las situaciones de conflicto familiar era en aquel entonces un instrumento pionero

una ayuda en la resolución de las situaciones de conflicto familiar una vez producidas las separaciones o divorcios y donde se pretendía especialmente la protección del menor y la ayuda para resolver gran cantidad de situaciones de tensión y conflicto posteriormente preguntas interpelaciones comparecencias y alguna otra pnl

a partir del dos mil uno se pusieron en marcha por iniciativa social

en dos mil dos fue la apertura del punto de encuentro de bilbao y así sucesivamente

desigual y con distintas dificultades de tipo material y financiero con el tiempo y las necesidades este recurso

su regulación llegó años después con el decreto ciento veinticuatro barra dos mil ocho de uno de julio gaur esan dezakegu kontsolidatutako zerbitzu publikoa dela

original de eh bildu a pesar de que en el comienzo de su intervención la señora goirizelaia ha matizado cuál es la justificación

de la propuesta sí que hay algunas cuestiones en las que discrepamos aunque sí

porque dice mucho de la evolución que han sufrido los puntos de encuentros se dice concretamente que en el momento en que se pusieron en marcha se tomaron en consideración las circunstancias existentes

y resultan totalmente escasas las medidas que se tomaron entonces pudiera parecer de esta afirmación que la situación de los puntos de encuentro familiar es la misma que en dos mil uno momento en que empezaron a implantarse y nada más lejos de la realidad

hay que poner de manifiesto que desde que se pusieron en marcha en dos mil uno se ha producido una importante evolución en muchos aspectos en primer lugar desde el punto de vista competencial

luego se le sumaron la iniciativa municipal y foral hasta que en el año dos mil diez el gobierno vasco se hizo cargo de los puntos de encuentro excepto el municipal de barakaldo

a través del departamento de empleo y asuntos sociales según el decreto regulador del dos mil ocho

en el departamento de justicia actualmente en el departamento de trabajo

también desde el punto de vista de los casos atendidos en creciente demanda si en dos mil siete por poner una fecha se atendieron a doscientos sesenta y cinco familias con setecientos noventa y cinco personas atendidas en dos mil quince últimos datos disponibles

mil sesenta y cuatro menores en tercer lugar desde el punto de vista de la financiación en dos mil dos comienza a destinarse dinero público para los puntos de encuentro a través de subvenciones pasando por una época de financiación mixta con aportaciones de los ayuntamientos de las diputaciones y gobierno hasta llegar a una consolidación financiera por parte del gobierno vasco

y a partir del dos mil quince hasta este año con partidas

de la consejera en dos mil nueve y hemos de decirle que como usted bien conocerá que en enero del dos mil diez se puso en marcha el nuevo punto de encuentro familiar de donosti en julio del dos mil quince el nuevo punto de encuentro familiar de gasteiz en lakua con una inversión superior a los doscientos mil euros con el doble de espacio que el anterior que está ubicado en la plaza de españa con moderno equipamiento

y como le ha dicho la señora castelo en breve este año se pondrá en marcha el nuevo punto de encuentro familiar de bilbao

ciento cincuenta metros cuadrados más que el de uribarri y dotado de los más modernos sistemas de seguridad y

por lo tanto no es cierto ni justo manifestar que la situación actual es la del momento en que se pusieron en marcha los puntos de encuentro como se dice en la justificación a pesar como digo que luego la matización o la exposición de la señora

porque como se puede comprobar esto no es cierto sino que en los último años

para la correspondiente mejora del servicio y la adaptación a la demanda creciente demostrando la preocupación y ocupación del gobierno en esta materia hoy en día los cinco puntos existentes si bien uno como decía la señora castelo es doble porque atiende el de portugalete a portugalete y zalla enkarterri los cinco puntos de encuentro existentes

son los mismos que en el dos mil trece sí son los mismos en cuanto a cantidad pero como hemos visto no en cuanto a calidad y eso creo que es importante para la atención de las personas

son espacios neutrales de uso gratuito y temporal que el gobierno vasco pone a disposición

para que puedan visitar o intercambiar a los y las menores de edad cuando hay una orden judicial son espacios que ofrecen las máximas garantías de seguridad en situaciones de ruptura del núcleo familiar sin acuerdo con conflicto malos tratos etcétera además como bien han dicho en ellos trabajan equipos psicosociales multidisciplinares y expertos que vigilan

y efectivo emocional a las personas menores de edad y realizan una labor de intermediación a fin de facilitar la normalización de las relaciones del menor con ambos progenitores

prozesuetan familia arremenak mantentzea y por otro lado tampoco nos parecía

al manifestar a priori que la distribución de los puntos de encuentro resultan insuficientes que no es suficiente para responder de forma adecuada a las necesidades actuales

presentada en esta cámara la pasada legislatura donde se solicitaba la creación de un punto de encuentro

a la vez que se instaba a realizar un análisis global sobre las necesidades de este servicio en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco vamos a ser serios y rigurosos y vamos a encargar primero ese análisis al competente para ello que no es otro que actualmente el departamento de trabajo y justicia

que como se ha mencionado sabemos que se está realizando y luego veremos las conclusiones las necesidades en su caso y las posibilidades de mejora que seguro que existen

con lo positivo con el acuerdo la unanimidad de todos los grupos de esta cámara y también a la que finalmente se ha incorporado para buscar esa unanimidad un aspecto mencionado por elkarrekin podemos

en el sentido de expresar tal y como recoge la recomendación general del ararteko uno barra dos mil trece la preocupación por la falta de celeridad en la puesta en marcha de las derivaciones judiciales

que también en las comunicaciones judiciales a los puntos de encuentro para finalizar me gustaría hacer un reconocimiento a la labor de las personas que están trabajando en estos puntos de encuentro que tan importante labor realizan a la hora de canalizar situaciones difíciles en parejas rotas que normalmente quienes pagan los platos rotos son los hijos y las hijas contribuyendo a aliviar esas situaciones y a poder canalizar la relación de los hijos e hijas con sus progenitores garantizando

por qué traemos esta iniciativa hoy al parlamento vasco

traemos esta iniciativa porque hay tantas razones como infinitos casi casos de corrupción del partido popular esa sería una primera razón suficiente en nuestra opinión para traer

a que se posicionase el parlamento vasco ante la alarmada opinión pública por tratarse del partido que se sitúa en el gobierno

sino una corrupción estructural también porque el principal partido de este parlamento y principal sustento del gobierno vasco

este partido popular se pueda mantener

en estos momentos no se trata solo de condenar execrables casos de corrupción en el partido que preside el gobierno del estado el partido popular lo cual ya es suficientemente grave en nuestra opinión como para que el parlamento vasco

sobre todo cuando ese partido como decía ha conseguido aprobar esos presupuestos con el apoyo del principal partido de esta cámara y contra la opinión mayoritaria no solo ya de la sociedad vasca sino también contra la opinión mayoritaria

parlamento nosotros queríamos aprovechar también para preguntar al partido nacionalista vasco si las cuestiones que plantea en su enmienda y en la que se reconoce estas características de corrupción profunda

en el estado si ustedes creen que eso es compatible con sostenerle en estos momentos en el gobierno del estado pensábamos que en este momento y con las últimas informaciones aparecidas también en el último mes desde que nosotros iniciamos

ni tan siquiera se trataba ya solo de denunciar y reprobar la corrupción estructural que recurra al partido popular a todos los niveles con cientos de casos graves de corrupción

y por la que han sido condenados importantes altos cargos populares incluidos sus anteriores

entendemos es aún más grave el partido popular ha desarrollado durante décadas toda una trama criminal para sufragar su maquinaria electoral a costa de dinero público

esta trama criminal es una auténtica mafia organizada que ha utilizado su posición privilegiada en diferentes gobiernos a todos los niveles

autonómicos y también en el gobierno del estado para llevar a cabo sus actividades delictivas saqueando lo público para mantener sus redes clientelares

y llenar los bolsillos particulares de no pocos chorizos de cuello blanco mediante auto del juzgado de instrucción número cinco de la audiencia nacional

el próximo veintiséis de julio nada más y nada menos

tendrá que declarar en un caso de corrupción de su partido según el auto esta citación se produce porque el partido popular procesado por ese caso se negó a prestar ninguna declaración respecto de los hechos a raíz de esa citación y de posteriores actuaciones judiciales y de fiscales hemos entrado en una situación

en la que cada día aparecen nuevos investigados detenidos querellados o procesados relacionados con el partido popular o con las empresas corruptoras de estos situación insostenible para mariano rajoy y su gobierno si no fuera porque en estos momentos el pnv ha decidido suministrarle una bombona de oxígeno política al aprobarle los presupuestos del estado el reciente caso lezo uno de tantos casos de corrupción por los que se juzga al partido popular ha puesto de manifiesto de manera especialmente visible que este partido hace de la fiscalía anticorrupción y de otras instituciones del estado para entorpecer las investigaciones abiertas contra su partido así

del partido popular iniciándose un procedimiento que afecta a más de sesenta personas entre ellas al exministro de aznar eduardo zaplana al presidente de inassa

los encausados lo están siendo por delitos de malversación organización criminal cohecho

blanqueo de capitales prevaricación y fraude también ha habido registros y actuaciones contra empresas como la constructora ohl

y sus directivos como el conocido empresario villar mir o javier lópez madrid de quienes se investiga si han pagado al partido popular

en mordidas o si le han financiado con más de setecientos mil euros en el caso de indra

los intentos de ocultarla o de dar apoyo a las personas implicadas desde las instituciones y poderes del estado utilizándolos para ello

estado de derecho y de la arquitectura institucional especialmente alarmante es el uso que el partido popular está haciendo de la fiscalía y de la fiscalía anticorrupción con maniobras para obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción de su partido

una semana ex fiscal jefe de la oficina anticorrupción manuel moix intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados nada más llegar a su cargo en febrero de este mismo año e intentó además que no tuvieran lugar los registros

los fiscales que llevan dieciocho meses investigando este asunto tuvieron que invocar el artículo veintisiete del estatuto de la fiscalía para convocar la junta de fiscales anticorrupción donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe y apoyó la práctica del registro

pidiéndole que renuncie a su plaza en madrid y vuelva a su puesto

para estas actuaciones moix ha contado con el aval del fiscal general del estado

el mismo que impidió que el ministerio público acusara al expresidente de la región de murcia pedro antonio sánchez también del partido popular

que sí veían motivos para la imputación es también el que sustituyó a los fiscales encargados del denominado caso del tres por ciento es extremadamente grave que tal y como figuran en los autos ignacio gonzález y eduardo zaplana intercambiaran mensajes telefónicos en los que aseguran que han hablado con el ministro de justicia

sería bueno y serio que se llama moix bueno y serio para sus intereses claro está

manda apoyo al delincuente ignacio gonzález con un mensaje claro

un fuerte abrazo ojalá se cierren pronto los líos al más puro estilo de mariano rajoy se fuerte

ni las actuaciones de la fiscalía ni las de los ministros de justicia y de interior han supuesto ningún reproche por parte de mariano rajoy en su eterna actitud de esconder la cabeza como ha hecho desde que preside el partido popular y el gobierno del estado no hacer absolutamente nada para luchar contra la corrupción en la que su partido es el máximo protagonista no se trata de un caso más ni de un caso aislado como le gusta justificarse al partido popular

ha sido protegido por la fiscalía anticorrupción y por la fiscalía general del estado que ha utilizado las instituciones para defenderse de la justicia y ha utilizado la propia justicia para defenderse de la justicia el primero

era solo el último capítulo de quien nunca tuvo que ocupar ese cargo un jefe de la fiscalía anticorrupción que ha estado al servicio del partido más corrupto de europa un hombre considerado por ignacio gonzález como uno de los suyos en la famosa conversación telefónica

parece ahora que lo más grave es que el señor moix tuviera una empresa en panamá esto es muy grave pero para nosotros hay algo todavía peor es que dos presuntos delincuentes ignacio gonzález

actualmente en la cárcel el primero digan en una conversación grabada que moix es el fiscal anticorrupción que necesitan para protegerles una conversación

le constaba al fiscal general del estado al señor maza porque la unión progresista de fiscales y otros fiscales le hicieron saber que existía ese pinchazo

estamos ante una auténtica violación flagrante de la división de poderes con objetivos partidistas y delictivos por parte del gobierno que gobierna el estado

me dirijo de nuevo al partido nacionalista vasco y por eso nosotros también trajimos una iniciativa relativa a los presupuestos generales del estado hace unas semanas

a este tipo de gobierno hablamos del uso de instituciones públicas y de ministerios para proteger a delincuentes para proteger a corruptos hablamos del uso del ministerio de justicia de quien ha dependido en última instancia el nombramiento de moix

clave en una trama más compleja la estrategia del partido popular ante los enjuiciamientos por corrupción es utilizar su situación en el gobierno

hay quien dice que el pp cuando le va mal un juicio no cambia de abogado cambia de juez nosotros pensamos que eso está pasando de verdad recientemente en la audiencia nacional

recusados en el pasado por su cercanía al partido popular hasta dos mil dieciséis más de ochocientos cargos del pp imputados en treinta y uno casos de corrupción

o la púnica son solo algunos de los más conocidos a los que se han sumado otros como la operación el propio partido popular ha sido imputado por borrar hasta treinta y cinco veces los discos duros de los portátiles que utilizaba su extesorero

b del partido eso le supuso el honor de ser el primer partido imputado en democracia al primer partido imputado en democracia también

en estos momentos hablamos de una organización criminal y no lo digo yo lo ha dicho la guardia civil es un partido imputado por financiación ilegal

por defraudar malversar o mentir es un gobierno que censura coacciona encubre desampara maltrata y engaña son un peligro público

la mujer de arias cañete el ministro soria no hay udef para tanto chorizo

y tratar de paliar los previsibles efectos negativos

que salpican a esta formación que aún se están investigando y sobre los que se seguirán sucediendo las vistas orales en diferentes tribunales en los próximos meses

esté ahora mismo o llegase al gobierno pero en estos momentos solo se sostiene en él gracias a los

y es especialmente sangrante en nuestra tierra que lo haga gracias al apoyo del partido nacionalista vasco cómo se puede estar

como un partido corrupto y que utiliza además las instituciones a su antojo para obstaculizar la justicia en su propio beneficio

acuerdos económicos y los presupuestos nada más y nada menos que los presupuestos generales del estado sin los que tendría absolutamente complicada su situación y su continuidad

del gobierno seguramente el partido popular saldrá aquí a intentar defender su

yo creo que en estos momentos es complicado y por eso seguramente pondrán el ventilador

me hablen de venezuela o de cuba creo que el partido socialista está de acuerdo

pero creo que no lo podrá expresar por su acuerdo con el partido nacionalista vasco y creo que el partido nacionalista vasco

lo que dice en su enmienda tiene una oportunidad hoy excelente de votar esta iniciativa tiene una oportunidad excelente

mariano rajoy nosotros les invitamos a ello eskerrik asko

mahaiburu andrea legebiltzarkide guztiak egun on creo que hoy es menester empezar con los versos de quevedo

nace en las indias honrado donde el mundo le acompaña viene a morir a españa

bachiller en mentir licenciatura en engañar doctorado en robar

espainiako merkatu eta lehiaren komisioak la comisión nacional de los mercados y de la competencia ustelkeriaren urteko kostua

miaketetako bat ez egitea proposatu zuela pero lo peor es la impunidad porque el señor moix ha dejado de ser fiscal jefe anticorrupción no precisamente porque se le haya cesado

seguramente para seguir siendo ese fiscal más preocupado en entorpecer investigaciones de corrupción que en impulsarlas desde luego podría ser este un punto en el que solo hablemos

pero cuando hemos intentado transar una moción conjunta no ha sido posible porque los grupos del partido nacionalista vasco y el partido socialista no querían reprobar el carácter estructural de la corrupción optaban más por mostrar su preocupación si compartimos la preocupación la cuestión es que esa preocupación nos lleva a reprobarlo

y aquí es donde no hay posibilidad de acuerdo porque negar la realidad es fomentar y facilitar que la corrupción siga

y esa era una novedad porque hasta ese momento la corrupción había sido más de tipo particular más que a nivel de organizaciones el análisis académico que se hace sobre la corrupción en españa señala y leo textualmente que se sustituyeron los enriquecimientos personales por una tendencia a la práctica irregular sistemática por parte de unas entidades políticas que aumentaban incesantemente sus necesidades de financiación siendo los mismos actores que generaban los actos ilícitos de los partidos sus principales beneficiarios los nombres que conocemos han sido básicamente personajes que actuaban presuntamente como intermediarios ente corruptores y la organización los secretarios del partido popular o bárcenas son un ejemplo o juan guerra en el caso del psoe

dice que ejercer el poder ha significado avaricia y dominación además el deterioro de la imagen de los partidos cuando todos a una salen en defensa del corrupto porque otra de las cuestiones son los indultos

se indultaron cuatrocientos nueve condenados por corrupción esto es actitud permisiva un detalle también que no es menor

y no por los organismos de control otra prueba de la permisividad del sistema la regulación de la financiación política en españa incluyendo las reformas de dos mil siete y dos mil doce sigue siendo notablemente defectuosa

señalan y leo textualmente están pensados para obstaculizar el conocimiento de las actividades que los partidos pretenden mantener ocultas porque respecto a la transparencia de ingresos y gastos de los partidos las contabilidades que estos presentan al tribunal de cuentas

ni tampoco integran todas las organizaciones que componen el partido las donaciones se debe informar de las mismas eso sí pero en la reforma de dos mil doce los legisladores convenientemente olvidaron precisar qué ocurriría en caso de incumplimiento tampoco olvidemos que el tribunal de cuentas no puede investigar a las empresas que colaboran con los partidos ni puede sancionarlas por incumplir su obligación legal de colaborar con él

no se muestre en sus informes muy conforme con el comportamiento anticorruptivo español y se queja

más que de la existencia o de una mejor o peor normativa penal y procesal de la poca eficacia de la persecución porque

fenómenos delictivos no se debe necesariamente a la falta de legislación al respecto sino a su falta de aplicación

también los indicadores más conocidos el corruption perceptions index de transparencia internacional el control of corruption del banco mundial o los international country risk guide

muy similares a medida que siguen saliendo casos españa ha sufrido una de las caídas más pronunciadas en los últimos años en los índices

españa ha caído siete puntos desde el dos mil doce y con una nota de cincuenta y ocho es uno de los países peor clasificados entre las democracias de europa occidental en noviembre

el ochenta por ciento de la gente opinaba que el gobierno no actuaba ante la corrupción ningún otro país de la unión europea alcanza esos niveles

gana por goleada el consejo de europa reprobó también la politización del sistema para elegir al poder judicial en dos mil trece cuando el grupo de estados contra la corrupción planteó a españa once recomendaciones para combatir mejor la corrupción entre los parlamentarios los jueces y los fiscales la institución manifiesta alarmada que los escándalos de corrupción política del país eran tan grandes que imponían unos deberes para intentar resolver la situación sin embargo los resultados de la evaluación del dos mil dieciséis que ninguna de las once medidas propuestas entonces ha obtenido una respuesta satisfactoria seis de ellas ni siquiera se han puesto en marcha indultos falta de investigación falta de interés de poner en marcha las recomendaciones por todo eso hablamos de actitud permisiva

el estado español está en la cuarenta y ocho tiene por encima países como brunéi

bután esto es lo que está consiguiendo la corrupción sistemática de los partidos

caso gürtel los papeles de bárcenas el caso palau el caso pujol todos los casos de los ayuntamientos tras la liberación del suel los pelotazos sistemáticos el ave los aeropuertos el caso saqueo el caso malaya

la operación púnica las tarjetas black las puertas giratorias

desde mariano rajoy hasta el último concejal de urbanismo están involucrados eta beste esaldi batekin nik ere bukatu nahi dut

uno de esos debates testimoniales que en los últimos tiempos nos viene planteando

o de una política creo que bastante desorientada hace no mucho ya debatimos aquí una propuesta

la que nos planteó eh bildu que hoy se ha estrenado citando a los clásicos españoles señora larrion una formación por cierto

haciendo del parlamento una prolongación del congreso de los diputados de españa

que sinceramente señor hernández a mí me parece una especie de moción de censura a rajoy adelantada probablemente para ambientar la que pablo iglesias defenderá el próximo trece de junio en madrid una moción sin posibilidades de prosperar porque ni les sale los números ni siquiera se presentó con intención de que

para poner en un brete al partido socialista con una idea hacer ver que el partido de ustedes el partido de podemos es la única alternativa a la derecha cuando en realidad

perpetuándose en el poder y simplemente describo hechos hace un año ustedes señores de podemos sus colerrigionarios en el congreso de los diputados le dieron catorce meses hace ahora

y votaron en contra con rajoy contra la posibilidad de un gobierno de cambio presidido por pedro sánchez y entonces hicieron posible la perpetuación de este gobierno de la corrupción y fueron parte del problema que hoy denuncian de la situación de emergencia que hoy vivimos

que ustedes han contribuido a mantener y perpetuar en el tiempo

creo que es demasiado fuerte el mejunje que nos ofrecen para tomárselo de un trago demasiado fuerte incluso para que se lo trague el autor de la iniciativa que en un arranque de cortesía hasta le ha llegado a ceder al partido socialista la iniciativa para que seamos nosotros

yo ignoro cuál es el grado de acuerdo que ustedes mantienen aquí

pero mucho me temo que con su forma de actuar va a ser un poco más difícil abrir los espacios de entendimiento aconsejables entre las dos principales fuerzas políticas de la izquierda española dicho lo cual añadiré que no tengo ninguna intención de esquivar el debate que ustedes

tampoco necesitamos consumir mucho tiempo en explicarnos porque nuestras posiciones son sobradamente conocidas de hecho la enmienda que presentamos con el partido nacionalista vasco es casi copia de la iniciativa que presentó el grupo socialista el diecisiete de mayo en el congreso de los diputados y que ustedes apoyaron y los señores del partido nacionalista vasco también

por todo lo que está haciendo su gobierno pensamos que no se pueden tolerar comportamientos tan corruptos como los que día sí y día también están dejando ver el gobierno del partido popular

para obstaculizar la acción de la justicia en las causas judiciales por delitos de corrupción de eso habla también nuestra enmienda apoyamos el acuerdo del pleno del congreso de los diputados que a iniciativa socialista el pasado diecisiete de mayo reprobó al ministerio de justicia al ministro de justicia pidió el cese del fiscal general del estado

así como del fiscal anticorrupción que como saben afortunadamente ya ha dimitido pese a la ardorosa defensa de su jefe

y entendemos también necesario que el señor rajoy dé cuentas de explicaciones de lo que sabe en la comisión parlamentaria adecuada que ayer mismo se ratificó

porque el autor de aquel célebre mensaje sé fuerte luis tendrá mucho que explicar a este país

dentro del congreso de los diputados y fuera del congreso de los diputados y eso es lo que recogemos como enmienda presentada conjuntamente con el grupo nacionalista a la propuesta

ha sido imposible pactar y que nosotros vamos a defender en su integridad hoy como hace un año la corrupción es un pesado lastre para este país porque afecta a la credibilidad del estado de derecho a la propia democracia y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus representantes políticos

quienes creemos en la política estamos obligados a denunciar la permanentemente allí donde se produzca o donde existan condiciones para que se produzca y además hacerlo con claridad

porque desgraciadamente no faltan quienes pretenden ocultar o disminuir este grave problema con maniobras nacionales de diversión los unos cubriendo su corrección indecente con la bandera de españa y los otros con la estelada y los unos y los otros poniendo decibelios

y desviando al final la intención sobre lo verdaderamente importante

la vida pública española porque es público y notorio que hay corrupción y hay corrupción seria más allá de las filas del pp y también hay que atajarla con decisión aunque por desgracia hay quienes piensan que cataluña por ejemplo el derecho a decidir lo cubre y lo tapa todo

es censurable pero entendemos también que la moción de censura es algo demasiado importante para este país como para manejarla de forma tan frívola como están haciendo ustedes porque es una verdadera frivolidad y una fuente de nuevas frustraciones sociales

solamente para revalidar un liderazgo personal de partido y no pensando en los ciudadanos españoles y por supuesto entendemos que una moción de censura como la que se pretende no se va a sustanciar en este parlamento sino en el congreso de los diputados aunque a ustedes les parezca otra cosa distinta muchas gracias

bat daukagu nuestro reglamento y referido en concreto a las proposiciones no de ley en esta cuestión es tremendamente clara o tremendamente claro con el fin de que el parlamento debata y adopte una decisión en torno a una

las proposiciones no de ley deberán presentarse mediante escrito a la mesa en la que figuren claramente el tema la justificación y el texto que se somete a la consideración de la cámara

determinado debate será por tanto esencial realizar un análisis previo de la cuestión planteada siguiendo esta metodología nos encontramos con esta proposición no de ley que hoy somete a nuestra consideración elkarrekin podemos cuáles son los puntos clave que en su título justificación

determinan esta cuestión uno la corrupción como hecho gravísimo dos

y el deterioro que ello supone para los fundamentos del estado de derecho tres los anteriores actos pero enmarcados en concretas causas específicamente en relación al caso lezo en madrid

es la cuestión sobre la que hoy debatimos no otra no otra desde el inicio de este debate o desde que llevamos

enmiendas también euskal herria bildu ha jugado al desenfoque de esta iniciativa el señor hernández también hoy

acordar es apuntalar a un gobierno acordar es apuntalar a un gobierno dice usted y habla de presupuesto del presupuesto

en el texto de su iniciativa el concepto presupuesto en ningún lugar no voy a insistir demasiado sobre la percepción que la propia sociedad vasca tiene respecto a los acuerdos tanto el presupuestario como el del cupo

casi el setenta por ciento de los que opinaron consideran que son acuerdos beneficiosos o muy beneficiosos esa mayoría social de la que hablan lo tiene claro nosotros también seguramente la señora larrión estaría leyendo el cis en esos momentos

en una negociación señor hernández

el que no hace muchos meses fue elegido en el congreso con los votos de los diputados del partido nacionalista vasco en contra no prosperó ninguna otra alternativa y no parece por el momento que vaya a surgir ninguna otra quién es responsable de esto

determinada cuestión objeto de este debate nuestra postura materializada en nuestra enmienda y ajustándonos estrictamente a lo que se plantea se basa en cuatro ideas básicas primera un rechazo explícito

buscan tapar o dar cobertura a dichos comportamientos este rechazo va acompañado de una co voluntad

como el que ha demostrado repetidamente el gobierno vasco por ejemplo en la adopción y aplicación del código ético un compromiso como ha demostrado también el propio partido nacionalista vasco las instituciones en las que gobierna junto con otros

por ejemplo euskadi es líder en transparencia en el ranking de comunidades autónomas que elabora transparencia internacional también son líderes en sus rankings respectivos las principales ciudades de la comunidad autónoma en segundo lugar la denuncia de las reiteradas injerencias del ministro de justicia para obstaculizar

la segunda de las ideas ya en el debate al cual se ha hecho aquí mención ya en el debate de esa moción en el congreso de los diputados el pasado dieciséis de mayo y con un contenido similar a la iniciativa que hoy tratamos el interviniente por parte del partido popular el señor rojas garcía planteaba a modo de descargo una serie de medidas que el gobierno de rajoy había tomado de cara a fortalecer la labor de la fiscalía unas medidas que entendemos oportunas esas medidas

y lo dijo en ese mismo debate en el congreso el portavoz en esa ocasión del grupo vasco el diputado mikel legarda

ha puesto en valor una percepción ciudadana previa de falta de independencia de la justicia por presiones políticas dirigida a favorecer a investigados de corrupción y fraude el problema de fondo es el modelo es la dependencia del ministerio fiscal respecto al gobierno central de turno de nada vale

si el que dirige y ordena el trabajo de esos nuevos fiscales es nombrado por el gobierno central y está constantemente supeditado

lo que procede y es lo que pedimos es una reforma de fondo del sistema judicial del estado que garantice la independencia

y fiscalía tercera y al hilo de la moción que citaba antes aprobada en el congreso el dieciséis de mayo lo que nosotros proponemos es

apoyamos la moción del congreso porque estamos de acuerdo con lo q plantea y quiero subrayar esto porque creemos que ese

es el foro correspondiente para ello todos los grupos aquí presentes tenemos representación propia en el congreso y ese ese es el lugar donde

y donde puede y debe ejercerse una labor de control efectiva más que efectista a la labor del gobierno del estado en dicha moción se acordaba por un lado la reprobación del ministro de justicia

tanto del fiscal general del estado como del fiscal jefe de la fiscalía especial contra la corrupción pidiendo también que fuese cesado y el segundo removido bien parece que

dimisión del señor moix dimisión eso sí precipitada por un extraño caso ligado a una empresa radicada en panamá la cuarta y la última idea que centraba nuestra enmienda está referida a la necesidad de que el presidente del gobierno tuviera una actitud transparente para con la comisión relativa a la presunta financiación

partido popular dando cuenta de todas aquellas actuaciones y hechos sobre los que tenga conocimiento esa es nuestra postura la que hemos defendido en el congreso lugar del control efectivo de aquel gobierno y la que desde aquí

de control de aquel gobierno apoyamos señor hernández y quería recuperar la idea de determinación del debate

usted nos trae su iniciativa qué es lo que nosotros hacemos en primer lugar analizamos lo que nos plantea en segundo lugar lo ordenamos

en tercer lugar clarificamos es decir dónde se hace el control qué es lo que podemos hacer nosotros en el congreso se están recogiendo cuestiones como acuerdan la reprobación nosotros lo que hacemos es apoyamos ese acuerdo que se

eso no significa que no seamos contundentes además de eso lo que hacemos es actualizamos

la moción del dieciséis de mayo señor hernández reconozca que nuestro texto es una versión muy mejorada del suyo pero sobre esta cuestión determinada

en la cuestión que usted nos plantea en principio no habría o no parecía que había ningún problema para avanzar pero aparece de repente la atracción fatal

su vértigo bildu eh bildu había salido ya del debate con su enmienda de este debate que usted plantea yo entiendo ese

y qué decide usted decide salirse también del debate usted se ha salido de su propio debate señor hernández

yo desde luego no lo entiendo eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi la verdad es que tengo que confesarle señor hernández que me había preparado unas notas por aquello del rigor parlamentario intentando aportar algo de información incluso intentar esto suele ser lo más difícil aportar algún tipo de argumento

a nuestro juicio manido no manido porque deje de tener importancia y porque no haya que debatir sobre la corrupción y sus consecuencias sino porque sus argumentos son tan previsibles y son iba a utilizar un adjetivo calificativo

que lejos de intentar aportar algo al debate público lo que intentan es arrimar el ascua a la sardina particular de cada uno en este caso

venía con cierta esperanza con cierta esperanza de ver algún argumento sólido que más allá del insulto más allá del adjetivo calificativo sin ningún tipo de sustento más allá de algún argumento

pero no hemos tenido la suerte hoy de conocerlo esto de información en prensa dicen que leímos que parece que pues cuando se está hablando de la dignidad como se está hablando de instituciones

lo mínimo que se puede exigir y pedir luego hablamos de la política

donde aquí no se viene a asaltar los cielos sino que se viene a intentar aportar

de interés a los debates públicos claro usted se preguntaba

y claro alguien podría pensar que la intencionalidad de podemos

es la de utilizar esta proposición no de ley es la de utilizar esta cámara para abundar en un linchamiento político hacia quienes hoy representamos aquí el partido popular pero en general hacia la deslegitimación

lo que plantea podemos algo más de fondo a lo que se suma también la señora larrion como nos lo ha reconocido y como lo ha dejado entrever usted ha sido en algunos pasajes de su intervención algo más sutil pero aquí lo que está haciendo es una enmienda a un sistema democrático y de derecho que es el que representa nuestras instituciones y que representa a españa

que representa esta cámara es un cuestionamiento profundo de los cimientos sólidos que nos han permitido progresar y convivir es un cuestionamiento de las instituciones no solo de las de control

profundo y absolutamente universal de la judicatura de la magistratura de los partidos políticos salvo el suyo

un cuestionamiento absoluto de las instituciones representativas que tienen errores y fallan por supuesto que sí

que el sistema tiene grietas a través de las cuales los corruptos aprovechan las oportunidades que les brindan esas grietas para enriquecerse o para ascender socialmente de una manera ilegítima

pero que esas grietas no son el sistema sino es una representación de lo que el sistema falla evidentemente y que tiene elementos de corrección y de elementos de reacción como estamos viendo

con sus huesos en la cárcel de manera preventiva y otros cuando terminen en los juicios orales que todavía no han terminado de manera definitiva no me cabe la menor duda

por lo tanto nos encontramos efectivamente contra un intento de linchamiento y deslegitimación de una opción política que es la que representa el partido popular sin solución de continuidad con trazo grueso y aquí vale todo

pero también nos encontramos con un cuestionamiento del sistema propio ya sea en este caso

porque podemos va de muy revolucionario pero no se atreve a tocar el verdadero poder de euskadi que lo representan ustedes y lo digo sin ánimo peyorativo créanme

que ustedes evidencian en cada oportunidad que tienen pero de las cosas más importantes no sé si voy a decir alguna

verdadero interés en compartir con ustedes es en relación a la intervención de la señora larrion

la figura de la pregunta retórica y decía la señora larrion qué es corrupción y se respondía

no tan retórica pero usted no tenía una respuesta tan evidente hace tiempo le preguntaban reconoce usted a eta como organización terrorista

y usted respondía es una pregunta concreta que no tiene una respuesta de sí o no

y porqué creo que usted no tiene ninguna legitimidad para dirigirse a esta bancada y acusarnos y desde luego juzgarnos desde el punto de vista ético ni moral

que la mayor corrupción ética y moral que puede existir es quitarle la vida a una persona de una manera injusta e ilegítima es una corrupción que no tiene ningún tipo

pero creo que no admite debate ni discusión usted no cree eso usted cree y defiende que hay determinadas circunstancias en las que se le puede quitar la vida a un ser humano y que además eso tiene una justificación y una explicación política eso le inhabilita

como corrupción usted cree que extorsionar a un empresario a un comerciante usted cree que eso esa extorsión se llama impuesto revolucionario nosotros creemos que es chantaje terrorista

a nosotros no nos sirve porque usted no tiene legitimidad moral ni política

en el ejercicio público y desde luego de nuestra honradez a lo mejor si hace ese recorrido a lo mejor si hace ese recorrido y sale aquí luego y dice qué es corrupción y dice

el terrorismo es corrupción ética y moral a lo mejor empezamos a equiparar los planos de debate pero como decía antes podemos está en una estrategia

es una estrategia que no tiene del todo que ver con euskadi es una estrategia nacional incluso me atrevería a decir que es una estrategia que está enmarcada en una estrategia internacional

los corruptos por un lado pero también la incertidumbre generada a través de la crisis económica para excitar las pasiones más bajas y para buscar enemigos

política y hoy lo hemos tenido oportunidad de escuchar también hoy en primicia no nos ha hecho falta ver la televisión para escuchar al señor iglesias y al señor monedero sino que el señor hernández

alumno a intentar reproducirlo yo creo que sin la brillantez del señor iglesias pero usted hace méritos y yo creo que lo conseguirá si insiste por esa vía

supeditada a los intereses de su dirección nacional en madrid me parece legítimo

vista cansada señor hernández porque claro está muy bien que vean lo que sucede a quinientos kilómetros y desde luego yo le puedo asegurar que tanto yo como el resto de mi grupo parlamentario

proposición no de ley aparte de otras muchas cosas es profundamente torpe no solo por la redacción

porque tanto usted como yo sabemos que hay motivos para poner el ventilador pero me interesa más ahondar en esta cuestión profunda

lo verdaderamente importante el poso político que ustedes quieren que siga propagándose esta es una cámara

en los que se debate donde los partidos políticos al menos a mí me gusta interpretar la política así venimos a intentar aportar algo de

algunas veces para intentar aplacar los ánimos que pueda haber en la calle la incertidumbre los miedos las amenazas que una parte de la población puede sentir y hay otro tipos de políticos que vienen a esta cámara al contrario a excitar esos miedos

sino a destruir ustedes vienen a señalar no a comprometerse ustedes vienen a hacer un discurso de trazo grueso

y no vienen a intentar aportar algo de detalle en este debate ustedes buscan un enemigo en este caso el enemigo necesario es el partido popular

yo prefiero que la política se desarrolle en otra dialéctica no en la de amigo o enemigo pero ustedes son

sin garantía y sin proceso juzgan es más han convertido el proceso en la condena

como se ha conseguido subvertir el debate político e institucional en el que estos momentos en españa en estos momentos también en euskadi y en esta cámara lo que se está procediendo es a un debate

es la condena y esto es absoluta y profundamente antidemocrático absoluta y profundamente fascista que

es profundamente antidemocrático y fascista porque usted ha dicho que hay una trama criminal

y usted ha dicho que somos una amenaza social y usted no tiene la talla suficiente para decirnos eso a quienes hemos demostrado coraje honradez y valentía a lo largo de toda nuestra trayectoria política
en defensa de unos ideales con absoluta libertad y usted lo ha dicho en esta tribuna y lo mínimo que puede hacer isiltasuna mesedez

a lo mejor usted dentro de unos años lo consigue hacer esfuércese pero usted no tienen ningún derecho a hablar en ninguno de estos parlamentarios en esos términos y lo ha hecho

por lo tanto amaitzen joan sémper jauna termino señora presidenta lo que no vale es tener

cuando se reciben también las críticas y termino señora presidenta compartiendo con ustedes un dato que es objetivo ya sé que no importante los argumentos y no importan los datos ya lo sé pero me resisto

manifestó que la percepción que ha podido trasmitirse de una fiscalía plegada a los intereses políticos no se corresponde con la realidad ya sé que los fiscales ustedes tanto los magistrados como los jueces como las instituciones como el resto de los partidos políticos no le merecen una credibilidad pero estos son datos objetivos del unión progresista de fiscales

acusar al ministerio fiscal de prevaricación así en términos generales de prevaricación actuando en virtud de los intereses de partido es acusar de un delito penal al ministerio fiscal

y lo cual resulta en sí mismo una absoluta esquizofrenia política porque si estamos teniendo oportunidad de ver juzgado y pasando por los tribunales a personas a hombres y mujeres acusados de importantes y delitos gravísimos

es porque la fiscalía ha trabajado es porque los magistrados hacen su labor y porque todos y cada uno de los corruptos no le quepa ninguna duda

o de podemos y acuérdese de este día y de esta fecha acabarán dando con sus huesos en la cárcel muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

señor sémper hablar de causa general

donde se fusilaron a mis camaradas me parece bastante fuera de tono todo lo que nosotros

aquí es nuestra más sincera opinión de lo que está pasando

en la calle de lo que está pasando y es la opinión de muchísima gente no solo a quinientos kilómetros

aquí y nuestra labor nuestra labor la de mi grupo parlamentario que vuelvo a tener que recordarles se llama elkarrekin podemos coalición de tres organizaciones nuestra labor es venir aquí

y nuestras ideas y no le tenemos miedo a ningún debate y a traer aquí ninguna cuestión que esté en la opinión pública

no han tenido ustedes que sacar venezuela y han preferido sacar eta era todavía más fácil qué tenía que ver hoy eta en este

utilizando esa cuestión y más sabiendo que la iniciativa la trae un grupo podemos que no tiene ninguna duda de moralidad respecto a esta cuestión y nosotros sí tenemos la talla moral para traer aquí un debate sobre la corrupción no de usted ni

al lado de usted sino del partido popular como estructura como organización que es a lo que yo me he referido y que es en nuestra opinión sí

como una trama mafiosa y es verdad que yo no tendré el desparpajo de

de mi coalición ni lo pretendo pero creo que he conseguido que hoy aquí todos los grupos lógicamente menos el suyo lógicamente eso no lo esperaba

que el partido popular no solo es un partido corrupto sino que utiliza las instituciones y por lo tanto los poderes del estado en su defensa y en su beneficio nosotros no pretendíamos que el partido socialista dijera amén a nuestra iniciativa ni mucho menos pretendíamos ponernos

en nuestra iniciativa que acordar con el gobierno del partido popular los presupuestos generales del estado sea apuntalarle eso lo digo yo

no está en la iniciativa porque pretendíamos sacar adelante la iniciativa pero el punto de fricción

que era el objetivo de nuestra coalición es el que ha mencionado también la señora larrion por cierto yo no tengo ningún vértigo a no pactar

en esta cámara a raíz de un debate sobre la negociación colectiva pero como decía la señora larrion

era el punto cuarto de la transacción que finalmente ustedes no han firmado con nosotros el punto en el que habla que los poderes del estado que distintos poderes del estado han actuado con permisividad con una redacción además que realicé yo

porque no hablo de todos los poderes del estado hablo de distintos poderes del estado y yo creo que si todos estamos diciendo que por ejemplo

en su propio beneficio no es eso que los poderes del estado tienen permisividad ante los casos de corrupción permisividad es poco la palabra por eso yo creo

no tenemos problema en mi grupo en votarla por puntos

si ustedes están de acuerdo en los otros tres puntos que efectivamente son muy parecidos a su enmienda

y porque recogí todo lo que me plantearon partido nacionalista vasco y partido socialista y recogí todo lo que pude de lo que me planteó eh bildu

yo le estaba viendo según le hablaba el señor sémper que le había llegado el mensaje de sé fuerte borja y nos ha trasmitido aquí

es curioso es curioso que este punto que tendríamos que estar hablando y se llamaba tal cual y creo que además yo me he ajustado a hablar de la corrupción pues qué poquito le han dedicado algunos partidos a eso no evidentemente el partido popular que le toca sacar balones fuera

esa parte la entiendo pero sí un poco me ha sorprendido la actitud del partido socialista y el partido nacionalista que se han pasado la mayor parte de su intervención

hay que ajustarse al tema sin embargo buscamos todo tipo de formas para evitar hablar del tema

pero desde luego a hablar del tema de la corrupción del partido popular le han dedicado muy poquito y está en el vídeo se puede comprobar luego lo sumamos hombre me sorprende señor aiartza que no piense usted que yo leo la prensa internacional

y no solo eso leo el cis lo mismo que le he hablado precisamente aquí de los índices de corrupción europeos sí

a los que yo por cierto no he hecho ninguna referencia porque efectivamente puede ser que lea la prensa internacional pero también he crecido en este país podría haber sacado pero no he querido porque yo crecí leyendo eso en prensa

a la lonja de pasajes y precisamente no es donde he entrado ni quiero entrar porque hoy hablábamos aquí de la corrupción del partido popular y yo he extendido

de todas formas el señor pastor nos lo ha dejado claro no solo en la intervención cuando ha dicho que hay un binomio en la oposición que somos podemos y eh bildu lo ha demostrado cómo le ha ayudado en el sé fuerte no hablando del tema porque efectivamente hay que decir porque las cosas son así que aquí parece que el gobierno lo formen tres y desde luego el capote que se le ha echado

señor sémper ya le voy a pasar yo también un par de enlaces de entrevistas mías porque hoy no es el tema de qué opino de determinados temas pero no me va a llevar hoy ahí

ni un solo argumentos sólido yo le he dado en toda la intervención datos yo no le he juzgado precisamente le han juzgado otros le he dado los datos de implicados

en niveles de euros ha salido de la corrupción que sé que es la punta del iceberg seguro que hay mucho más le he dado de percepciones le he dado datos sobre todo como usted defiende a la labor del poder judicial que claro que funciona a veces entonces van y los indultan cuatrocientos nueve indultados claro que sí aquí no cuestionamos que nadie esté en contra de la corrupción precisamente de lo que hablamos es de los poderes del estado porque precisamente esa es la definición de corrupción

también que hay diferentes hay en nivel europeo hay en nivel estatal hay de muchos podemos darles los que quieran

lo que no tiene es la consciencia de que la corrupción sea la del funcionario de turno nadie

tiene que entregar una cantidad de dinero la corrupción está arriba la corrupción es estructural como usted dice

no no el análisis académico que tampoco es mío de la corrupción

de los grupos y habla precisamente que es estructural los partidos se financian de esa manera de eso es de lo que hablamos y no hablamos de uno o dos personas si cada vez que sale una u otra y además

no son los miles de nombres aquí ustedes están y tienen imputaciones y están llamados desde el presidente del gobierno su señor rajoy hasta el último no absolutamente todos concejal de hacienda y urbanismo que ha estado imputado

o sea es absolutamente sistémico es estructural ese es el problema

el greco precisamente el grupo de estados contra la corrupción con sede

precisamente se lo dice y les dice los fallos les dice dónde actuar y les dice lo que no han imputado si no es una cuestión ni de podemos ni de eh bildu se lo dice el ochenta por ciento de la gente se lo dicen todos los datos

yo de ustedes no espero una sola verdad no la espero de hecho me sorprende cuando la oigo pero desde luego de la corrupción y el partido popular creo que hay muy poquito más

señora larrion me sorprende porque la considero a usted una persona inteligente y supongo que habrá

en criticar las verdaderas intenciones de esta propuesta que en criticar la corrupción del partido popular dos folios para cada caso exactamente

una que la otra porque para hablar claro aquí hay intenciones declaradas e intenciones no declaradas cuando se hacen

con este tema exactamente igual y es doble ustedes

esa fantasmal moción de censura de la semana que viene del señor iglesias por un lado y por otro intentan nuevamente

al gobierno de coalición lo que ocurre es que a veces es una ventaja

las conocemos hace mucho de ustedes o de otra gente como ustedes hace mucho tiempo y en esas no vamos a caer nos cogen ya con la mili hecha desde hace mucho tiempo

presentar cuando tienen el pecado original de tener que presentarla porque ustedes permitieron

ustedes dos veces una detrás de otra votaron en contra del candidato por lo tanto ya que estamos

que retiren ustedes esa moción de censura y ya no se lo pido yo solo se lo pide gaspar llamazares baltasar garzón

cristina almeida martín pallín y sus propios socios en valencia de compromís

y después sentémonos a hablar de verdad con sinceridad y sin segundas intenciones de si es posible o no presentar una moción de censura de verdad que pueda llevarse adelante y en fin

le reconozco que ha sabido sortear el tema con habilidad

fundamentalmente al partido popular no voy a decir que a ustedes en exclusiva fundamentalmente al partido popular y una reflexión muy sencilla esto no es no lo ha sido nunca a pesar de que

una causa general contra el partido popular no no tiene nada que ver

judeo masónica como se solía decir en otros tiempos porque lo décimos nosotros y lo dicen otros partidos políticos de esta cámara y del congreso de los diputados

y los tribunales y muchos fiscales a los que les dejan por lo tanto yo les recomendaría que tengan ustedes un poco de sentido autocrítico y de humildad

el que le va a hacer comparecer en la audiencia nacional al señor rajoy verdad por lo tanto algo habrá que

respecto a lo que ha pasado y sobre todo respecto a lo que hay que hacer en el futuro para que no vuelva a pasar eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro señora larrion ya veo que no me ha atendido porque

solo he hablado de corrupción y en tres puntos que es lo que se planteaba corrupción como tal esos intentos de

la misma punto segundo y en tercer lugar esa cuestión concreta que se nos plantea en la iniciativa que

solo he hablado de eso no sé lo veremos en el vídeo tampoco ha leído nuestra enmienda estaba leyendo la prensa internacional y no ha leído nuestra enmienda lea nuestra enmienda y verá yo he leído la suya

lea nuestra enmienda y verá de lo que hablamos y con qué profundidad en cualquier caso sigo manteniendo

y sin duda alguna un desenfoque que oculta cierta obsesión hoy la hemos visto menos pero que cierta obsesión señor hernández hablaba usted de punto de fricción el punto de fricción no está donde usted ha dicho ahí no está el punto de fricción no el punto de fricción es que usted había determinado un debate

mire su enmienda también perdón mire su texto original usted había determinado un debate y usted en el último momento se evade de ese debate

señor hernández sí me gustaría dejar claro también que a nuestro juicio la mejor imagen sobre el control

y es lo que quiere la ciudadanía no el ejercicio efectista

efectivo no buscar la imagen sino realizar el control realizar el control la pregunta es ustedes su coalición realizan ese control

con una pregunta retórica es cierto algún portavoz más la ha comentado empezaba con una pregunta retórica de por qué traemos aquí esta iniciativa empezaba

tengo mi opinión usted la trae por encargo usted esta iniciativa la trae por encargo realmente

este texto estrictamente este texto que usted presentó estrictamente

en muchas y diferentes instituciones del estado en muchas y diferentes instituciones del estado con puntos y comas estrictamente ese estado

qué objetivo tiene el traerla aquí a mi juicio

como altavoz al servicio de ese madridcentrismo

lejos a nuestro juicio de la dignidad que supone o que tiene

del autogobierno vasco nosotros señor hernández hacemos política en madrid mirando a euskadi ustedes hacen política en euskadi mirando a los intereses de su partido en madrid por eso atendiendo a esta cuestión

y a esta realidad mantendremos nuestro texto inicial de

le digo con

no para intentar convencerla quizás si nos entiende a lo mejor

es que la corrupción es una lacra la corrupción es una lacra que no solo desprestigia a los partidos políticos por supuesto al individuo

no solo desprestigia al partido político que estas dos cuestiones iniciales a mi juicio son las menos relevantes allá ellos y sus consecuencias que pueda haber un corrupto en un partido político y que importa la reacción de la formación política antes que el corrupto determinante también a la hora de intentar evitar males mayores que provoca la corrupción sino que creo que la corrupción es profundamente negativa porque daña la credibilidad de los ciudadanos hacia sus instituciones y por eso condeno con absoluta rotundidad cualquier ejercicio de corrupción más

es cometido por alguien que milita en mi propio partido político y creo que tanto yo como el resto de mis compañeros hemos demostrado esta posición a lo largo de nuestra trayectoria política reciente cuando se nos ha interpelado sobre esta cuestión

cuando sucede en otros lugares y laxo justificativo cuando la corrupción la hacen los míos

eta extorsiona a un empresario cuando eta extorsiona a un comerciante no es un impuesto revolucionario como usted cree o defiende o justifica

cuando eta quita la vida a un ser humano no solo es un acto de terrorismo execrable que por supuesto sino que es un acto de corrupción ética y moral ética y moral mayúsculo y cuando usted es muy contundente con una corrupción y mira para otro lado justifica

social o políticamente esa que le acabo de enumerar usted pierde credibilidad y en cualquier caso pierde legitimidad para darnos lecciones a los demás eso es lo que he pretendido compartir con usted no es un y tú más

pueda reflexionar sobre ello con tranquilidad y llegar a una conclusión el señor pastor se preguntaba

algo habrá que hacer para que no vuelva a pasar bueno yo creo que efectivamente hemos aprendido

el conjunto de formaciones políticas aquellas que han estado más afectadas por casos de corrupción en sus filas entre las que está el partido popular y el partido socialista también otros que han tenido casos de corrupción

sido capaces de construir entre todos y que ha permitido un crecimiento y un beneficio para el conjunto de la población y de la sociedad y creo que esto estamos absolutamente convencidos todos y por eso la pasada legislatura en el congreso de los diputados se aprobaron un paquete de medidas que yo creo que es importante que las recordemos

la actitud con la que los partidos políticos ejercemos nuestra actividad política

responden hemos aprobado la ley de transparencia que en euskadi también estamos trabajando en esta línea la ley de reforma del código penal que castiga de una manera mucho más severa actos de corrupción como no había antes la posibilidad de que los partidos políticos puedan ser sujetos

necesario la ley de financiación de los partidos políticos y cualquiera que tenga alguna responsabilidad en partidos políticos saben lo que se han complicado por rigor y me parece absolutamente razonable la financiación

y la información que hay que otorgar no en vano ahora dos gerentes van a tener que ir cada año al congreso de los diputados a dar cuenta de las listas de su partido es decir yo creo que se han hecho cosas yo creo que sí hemos aprendido de lo que nos ha sucedido

cada uno que asuma su cuota de aprendizaje y sí creo que se ha transformado y que no nos va volver a pasar lo que nos ha sucedido estoy absolutamente convencido y porque creo también que ha habido un proceso

en el juego de estos señores y por eso yo creo que es importante que mantengamos la serenidad la contundencia en la crítica sin duda cuando se produce el evolución en otras filas y en las propias que eso suele ser más lo complicado

del juego que pretende deslegitimar las instituciones y el propio estado de derecho creo que seremos capaces de recomponer esa confianza dañada también en una parte de la ciudadanía hacia el ejercicio de la política de los partidos que evidentemente con cien con setenta y cinco

y no jugar a exaltar a los ánimos a exaltar

jugamos y estamos en esto de la política para generar estabilidad progreso porque la alternativa

fíjense lo que su anterior ejecutiva o creo que es la actual

consiguió impedir que hiciera el señor sánchez y es que podemos le plantea al señor sánchez en el año dos mil dieciséis para llegar a un acuerdo de coalición

le plantea lo siguiente literalmente al señor sánchez dice la elección de los jueces y fiscales debería producirse por consenso bajo la lógica

de que los equipos estarán necesariamente compuestos por personas capaces con diferentes sensibilidades políticas pero comprometidos con el programa

se exige a los jueces a los magistrados y a los fiscales adscripción política

con los principios del cambio si esto fuera así hoy muchos de los que están dando cuenta ante los tribunales quienes están siendo denunciados por la guardia civil por la policía

y quienes van a dar con sus huesos en la cárcel no estarían pasando por ese calvario personal y en algunos casos justificado y espero que además los que sean justificado les caiga un buen palo sino que estarían

de alguna referencia muy cercana a algún grupo de aquí campando a sus anchas y eso

con un consenso al que hemos llegado todos los grupos y en un consenso relativo

este grupo propuso respecto de la dificultad del transporte escolar en muchas zonas hay un decreto

y es un decreto que en la educación obligatoria dejaba sin transporte escolar

álava a niños y niñas que vivían entre dos y cuatro kilómetros del centro claro me dirán pues dos o cuatro kilómetros no es un gran trayecto

había un camino habilitado para ello a raíz de esa preocupación la presentamos aquí y puedo decir que hemos llegado a un consenso

y que no solamente incluye la educación obligatoria como planteábamos al principio sino también la educación no obligatoria

todos los estudiantes entre dieciséis y dieciocho años que estaban excluidos

por qué teníamos esa preocupación mire déjenme que les dé unos datos

de las cuales trescientos cuarenta y cinco mil viven en bilbao es decir el treinta por ciento

eso qué quiere decir que con el setenta por ciento de la población en la provincia tenemos una masa crítica suficiente para que el transporte público pueda ser deba ser abundante

e incluso no excesivamente deficitario que normalmente el transporte público siempre tiene un déficit en gipuzkoa

viven en la capital es decir tenemos al veinticinco por ciento

de la población viviendo en la capital y tenemos un setenta y cinco por ciento viviendo en otras zonas

igualmente puede mantener un transporte público no sostenible económicamente siempre con algún déficit pero que bueno que puede ser extenso dentro de la provincia y con una regularidad razonable y estos transportes públicos que digo en gipuzkoa y en bizkaia y con convenios en la diputación cobran muchas veces los traslados de los estudiantes

de la educación obligatoria parte de su coste corre a cargo del departamento de educación pero qué nos pasa en álava pues en álava viven trescientos veinticuatro mil personas es el territorio que tiene menor población

con la menor población y no solamente con la menor población

viven en vitoria el setenta y cinco por ciento de la población alavesa vive en vitoria quedando solo un veinticinco por ciento de la población para habitar y poblar el mayor

claro en esas condiciones el transporte público que es obligatorio es un transporte que difícilmente puede tener unas frecuencias y unos alcances

y como el transporte público lo financia la diputación pero aunque se haga cargo el departamento de educación en los otros dos territorios es un modo de acceder a los centros de enseñanza pues en álava tiene un gran hándicap

y aquí esto es importante por una razón porque estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho a la educación

son derechos fundamentales y cuando tratábamos de derechos fundamentales el primer principio rector no es la igualdad

el primero es la equidad es decir dar a cada uno lo que necesita para que al final todos tengan igualdad de oportunidades y a los estudiantes de álava

muchísimo más difícil y muchísimo más complicado y además en un territorio en el que vemos que se va extinguiendo

no accede a los mismos servicios que en la capital que me imagino que esa es la razón principal

es un territorio en el que tradicionalmente

se conoce por un tipo de economía gipuzkoa por otro tipo de economía pero cuál ha sido la economía

típicamente a álava pues la conocemos por su agricultura

y las patatas de álava que vamos siguen siendo una marca reconocida por el vino de rioja

que la población el territorio cuya economía

rural es el que se está despoblando claro yo creo que este es un tema transversal aparte de ser de derechos fundamentales es un tema transversal

todos los departamentos pero ahora estamos con la consejería de educación y el departamento de educación si deseamos que álava

ese éxodo del mundo rural y esa extinción de su vida

y uno de los servicios fundamentales lógicamente es el de la educación el de la capacidad de poder llegar a los centros de trabajo eso

en el territorio estoy hablando de álava porque es verdaderamente el ejemplo y el que más sufre esta falta de equidad

mucho menores pero que pueden estar en una situación parecida entonces a qué

bueno lo primero le pedimos al gobierno vasco que realice un análisis de cómo están las cosas pero bajo ese parámetro el parámetro de la equidad de poder dar

a cada uno lo que necesita no a todos igual porque la situación no es igual después le pedimos que revise la normativa porque la normativa actual

en los cuales con los cuales se solvente este problema entonces le pedimos que se revise

y mientras tanto le solicitamos que

en el decreto como es en la enseñanza obligatoria esos niños que viven

de los centros escolares en sitios en los que a veces no hay ni caminos y los alumnos y alumnas de dieciséis y dieciocho años pues que en tanto cambiamos se cambia el decreto la consejería cambia el decreto se llegue a un acuerdo

se llegue a un acuerdo entre el gobierno vasco y las diputaciones para que colaboren y garanticen esa equidad a todos los estudiantes afortunadamente todos los grupos de la cámara hemos suscrito ese acuerdo nosotros desde luego creemos

que cumplen objetivos primero le da un tiempo razonable al departamento de educación para que cambie su decreto y al mismo tiempo

provisionalmente pedimos la cooperación de otros departamentos y otras instituciones

y es que para consentir derechos iguales hay que dar a cada uno no lo mismo sino lo que necesita muchas gracias eskerrik asko bengoechea

llevamos varias semanas debatiendo intercambiando opiniones entre los distintos grupos parlamentarios en relación a la temática de hoy y nuevamente tratamos en este pleno ordinario esto es la situación del transporte escolar en los entornos rurales por un lado en el pasado pleno de control ya preguntamos a la consejera de educación

por otro lado este mismo martes hemos tenido la oportunidad de escuchar en la comisión de educación

y además la misma iniciativa que hoy tratamos se debatió en el pleno de juntas generales de álava el pasado treinta y uno de mayo es decir

en araba existe el dicho siete cuadrillas hacen a álava

de todos es conocido y yo misma al ser alavesa conozco de primera mano muchos de los problemas que existe en araba en relación al transporte escolar una gran diferencia entre las cuadrillas y vitoria gasteiz en la capital es donde se concentra la mayor parte de la población del territorio y cuenta con la mayor parte de las infraestructuras para la realización de las actividades de carácter deportivo cultural y social

las escuelas vascas tienen la obligación de dar respuesta y solución a las necesidades de las familias que como en el caso que nos ocupa una de las principales demandas que hacen

escolar sobre todo quienes viven en zonas rurales si bien es importante matizar que estos servicios escolares no deben considerarse como meramente asistenciales

este tipo de servicios escolares los presta al alumnado personal ajeno al centro educativo y su función es la de complementar la actividad escolar que la escuela debe organizar es evidente que este tipo de servicio son necesario para responder

y de los nuevos modelos familiares hoy en día la incompatibilidad de los horarios laborales y escolares o la transformación de las estructuras familiares ha provocado cambios en el reparto y la asignación de las tareas dentro del grupo familiar

a la hora de llevar a sus hijos e hijas al centro público educativo que les corresponde a nuestro modo de ver el servicio de transporte es un servicio

y de calidad y debe cumplir los mismos objetivos que el resto de servicios escolares desde el punto de vista educativo facilitar la formación integral y hacer más realizable el acceso a la escuela

universalizar el servicio estableciendo las medidas que garanticen el acceso a todo el alumnado que lo solicite facilitar la conciliación laboral y familiar

como ya hemos dicho con anterioridad ciertamente es responsabilidad de la administración educativa garantizar el transporte escolar a todo el alumnado que lo necesite

a través de ayudas o becas por ello el decreto sesenta y nueve barra dos mil quince del diecinueve de mayo sobre el transporte escolar del alumnado

vasca establece en su capítulo segundo los requisitos necesarios para tener derecho al transporte escolar entre ellos recoge

en el caso de alumnado de segundo ciclo de educación infantil educación primaria y primer ciclo de educación secundaria obligatoria

a cuatro kilómetros desde su domicilio en el caso de los alumnados de segundo ciclo de educación secundaria obligatoria

a las personas afectadas al centro público que le haya sido asignado dichas garantías de transporte será única y exclusivamente para el alumnado que acuda a los centros determinados en el mapa escolar las delegaciones territoriales analizarán y aprobarán en su caso las propuestas presentadas por los centros

y con autorización para su uso con el fin de coordinar y planificar la prestación del servicio la comisión solicitará asesoramiento informes técnicos y dicha comisión propondrá las medidas que estime adecuadas para la mejora del transporte escolar leída la normativa podemos decir que está bien sin embargo a la luz de los problemas y quejas que nos llegan necesariamente revisada la realidad es que nos encontramos con diversas situaciones que no se ajustan a la normativa pero que teniendo en cuenta que el acceso a la educación pública debería ser gratuito y accesible independientemente de dónde se viva claramente esta normativa debe ser flexible y debe orientarse a cubrir las necesidades reales y no a cumplir requisitos es por ello que uno de los puntos de la enmienda de la totalidad que presentábamos se centraba en hacer un análisis

de nuestra comunidad autónoma con el fin de detectar necesidades y dificultades concretas necesidades concretas como pueden ser el caso de aldaialde

pero además nos preocupa que no se cumpla la normativa vigente para garantizar el transporte escolar a las familias cuyo centro escolar de titularidad pública se sitúe a igual o más de dos kilómetros de su residencias

es por ello que el segundo punto de nuestra enmienda se centraba en cumplir la normativa vigente y garantizar el transporte escolar a las familias cuyos centros escolares de titularidad pública se sitúe a igual o más de dos kilómetros de sus residencias un punto que tras ver las enmiendas de la totalidad inicial de pnv y psoe

de su necesidad porque claramente es el gobierno mismo a cumplir la normativa lo cual nos parece evidente en definitiva vemos necesario revisar y adaptar el decreto sesenta y nueve barra dos mil quince pero también

algo que el gobierno también ve necesario sin embargo vemos que la solución pasa nuevamente por una cuestión de voluntad política voluntad que se muestra en el presupuesto es decir no vale que se apruebe la necesidad de adoptar normativas etcétera y a posterior se recorte en transporte escolar en los presupuestos de dos mil diecisiete de gobierno vasco aprobados se recortó la inversión de la partida de transporte escolar y acompañantes un tres coma cinco por ciento

a este recorte fue cito literalmente se trata de un de ejecución y nosotros décimos y por qué no se dan estos ajustes en las partidas de altos cargos el sistema educativo vasco para que sea de calidad necesita inversión necesita recursos y una buena gestión de los mismos pero lo más importante necesita voluntad política

de presentar una enmienda a los presupuestos del dos mil dieciocho para asegurar el servicio de transporte en los entornos rurales estaremos atentas y queriendo aportar con permiso del señor sémper

y sí resumir que en definitiva nuestro apoyo total al entorno rural a la dotación de recursos para el transporte escolar para el alumno de centros de titularidad pública que lo necesite voluntad política para reforzar la enseñanza pública y voluntad para revisar la normativa y adaptarla a la realidad

relativa a garantizar el transporte escolar para el alumnado que cursa enseñanzas

procedentes de entornos rurales el martes como ya se ha dicho aquí tratamos este tema en la comisión de educación con representantes de las asociaciones de madres y padres

para garantizar la igualdad de todos los alumnos y alumnas respecto al servicio de transporte escolar independientemente

que al fin y al cabo es lo que dice el estatuto de autonomía en su artículo dieciséis en la que

la materia relativa a los servicios educativos entre ellos el servicio complementario de transporte escolar

y ayudas con fondos propios asimismo la ley orgánica de educación señala como principio del sistema educativo la calidad de educación para todo el alumnado

la equidad palabra muy repetida por la señora bengoechea

a través de la educación la inclusión educativa la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal

que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales culturales económicas y sociales con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad

que hemos sido capaces de acordar pedimos al departamento de educación del gobierno vasco le instamos a garantizar el transporte escolar

procedente de entornos rurales en los términos establecidos en el decreto

repetidas menciones en esta tribuna pero nosotros entendemos que no solo el departamento de educación

dado el entorno del que estamos hablando sino que también la diputación foral de álava tiene algo que decir tienen que trabajar en conjunto eso es lo que venimos a plantear

de ayudas y subvenciones para garantizar de verdad esta equidad en el transporte escolar para todo el alumnado anteriormente mencionado contando

y como parece evidente que la normativa actual en materia de uso de transporte escolar no garantiza suficientemente el transporte escolar a todos los alumnos y esta debiera ser revisada

enmienda a que se produzca su revisión las modificaciones oportunas para resolver las necesidades del alumnado

por uno u otro en cada momento sino que quede meridianamente claro por qué se aplica y a quién

y si se quieren seguir formando en centros educativos públicos no debieran verse como ocurre ahora

o porque este es de tal precio que impide a la economía de las familias poder afrontarlo se debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos independientemente de donde residan

ni el departamento de educación ni la diputación foral quienes hagamos esa diferenciación entre el alumnado puesto que estamos aquí para garantizar el derecho a la educación de todos y todas esta situación fue la que ha sido denunciada y nos lo trasmitieron así en la comisión de educación

que alumnos de secundaria deben pagar por utilizar un bus que es gratuito

y los padres y madres como bien nos comentaron terminarán llevando a sus hijos o a institutos de vitoria o de amurrio o en el caso de la rioja alavesa

más económico que el que se les ofrecía por el departamento de educación por lo tanto nos parece importante que esté regulada la ayuda de transporte que se recibe por parte del gobierno vasco

para que ningún alumno y alumna se vean privados del transporte escolar

por lo que los temas de educación es casi un inédito acuerdo unánime que creo que casi podríamos poner un marco aunque yo

para que esta dinámica de ser capaces de traspasar las fronteras de nuestra ideología y concurrir en elemento común en un territorio común del interés ciudadano

mediante el transporte gratuito de autobús es un servicio que se ofrece a todos los alumnos de dos a dieciséis años todos reciben esa atención

sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco financiado por el departamento

precisamente fue modificado en dos mil quince para dotar de mayor seguridad jurídica al alumnado a sus familias y a los propios centros

además de intentar que el transporte llegue a todos los estudiantes de educación obligatoria

para recoger excepcionalidades para que sea garantizado por igual en él se establece que tienen derecho al transporte escolar los estudiantes de segundo ciclo de educación secundaria

y para los de segundo ciclo de educación secundaria la exigencia es de cuatro kilómetros sin embargo

para valorar los supuestos excepcionales y que aquellos alumnos que queden fuera del requisito principal de distancia puedan disponer de ese servicio como así se recoge

e en el que se señala que la excepcionalidad deberá ser explicitada y razonada con indicación de los concretos motivos en que se fundamenta y será revisada anualmente

a todo el alumnado independientemente de la distancia por lo que nadie queda fuera de este servicio

para tener derecho a ese transporte pero cuando se detecta algún caso es la delegación territorial la que la traslada a la comisión de seguimiento y a día de hoy todos los casos planteados

la comisión de seguimiento tiene como objetivo fundamental proponer las medidas que se estimen adecuadas para la mejora del transporte escolar en todas sus modalidades

teniendo en cuenta que una de las obligaciones de la administración es la igualdad de trato a todo el alumnado

en colaboración con la diputación foral de álava se presta este servicio

acerque a los estudiantes de educación secundaria obligatoria o bien hasta la parada de una línea regular de transporte escolar o hasta el propio centro pero además anualmente también se establecen asignaciones individualizadas becas para ese transporte escolar el departamento revisa todos los años los recorridos y los tramos de transporte de cara al año escolar siguiente para prever los contratos y tener en cuenta las excepcionalidades que se recogen en el decreto por ello creemos que el acceso al servicio de transporte escolar está garantizado en todas las zonas incluso en el supuesto de modificación del mapa escolar

en todos los decretos hay margen de mejora y por eso hemos firmado esta enmienda transaccional entre todos los grupos para mejorar las conexiones de las zonas rurales a los centros educativos no la voy a repetir porque ya se ha comentado aquí pero bueno comentaré que respecto al primer punto se pide un análisis de situación de esos centros y del transporte aunque esa tarea ya la realiza la comisión de seguimiento puesto que es su cometido no nos parece mal que se realice otro análisis las mejoras en el segundo punto se pide también la revisión de la normativa para que en caso de que haya que introducir modificaciones se contemplen el decreto contempla como ya he dicho esas excepcionalidades

tanto gobierno vasco como diputación para trabajar juntos para garantizar el transporte a los alumnos de la enseñanza no obligatoria puesto que esos no están incluidos en el decreto entonces

que esa educación debe partir de la colaboración

para mejorar esas excepciones besterik gabe eskerrik asko